gracias señora presidenta señor lehendakari recientemente el tribunal constitucional rechazaba la posibilidad de conceder a los condenados por el llamado caso bateragune

mantenerlos en prisión a la espera de la resolución del recurso de amparo presentado por la defensa ante esta resolución del alto tribunal usted señor lehendakari se apresuraba a expresar y cito literalmente que esas personas no deberían de haber sido encarceladas por esa razón

vivimos corresponde a los tribunales de justicia determinar las razones por las cuales las personas son objeto de encausamiento deben o no ingresar y permanecer en prisión

tienen que estar fundamentadas jurídicamente y sostenidas en pruebas concluyentes como democracia que somos las sentencias judiciales son criticables pero si no queremos judicializar la política esta crítica debiera sustentarse aunque fuese mínimamente en argumentos jurídicos

políticos además quienes ostentan cargos de gran representatividad como

deben acreditar un plus añadido de rigor y responsabilidad en cada una de sus declaraciones

si son razones jurídicas o meramente políticas por las que según usted el señor otegi y el resto de condenados

he realizado esta afirmación manteniendo el mismo criterio que defendía en septiembre de dos mil once por remontarme a unas de las últimas intervenciones sobre esta cuestión por no referirme a la que en el momento de la detección de las personas implicadas en el caso bateragune y también hice y lo hice con coherencia también en mi calidad de lehendakari

yo declaré dos cosas primero que era necesario que la izquierda abertzale pidiera públicamente a eta el abandono definitivo de las armas y el reconocimiento del daño causado y segundo

y en este contexto fue en el que yo expresé o afirmé que el caso bateragune era una piedra en el zapato y a pesar de esa piedra señora llanos a pesar de que sea derivada también de la ley de partidos políticos

de que yo hiciera estas declaraciones insisto hace ya año y medio en las que me reafirmo

de este anuncio mantengo el mismo criterio con más razón me pregunta usted

estos criterios corresponden a los abogados de la defensa de la acusación de la fiscalía y al propio tribunal sí lo que pido en todo caso es que el tribunal resuelva cuanto antes el recurso de ampara esto es también lo que he dicho y en todo caso señora llanos

jurídicos confrontados o contrapuestos como los que yo pueda tener

criterios jurídicos contrapuestos que yo no acepte o no acate o no respete como es en este caso la sentencia del tribunal o de los tribunales yo hablo señora llanos de principios pro derechos humanos pro derecho humanos como la lesividad la humanidad

afirmo señora llanos que estamos en otro momento político y social quiero pensar que es así pese a los debates que esta misma mañana hemos tenido

al tiempo de la política que es el tiempo en que vivimos señora llanos eskerrik asko

a hacer esta declaración pero simplemente por recordárselo el señor otegi fue condenado a seis años y medio de prisión por un delito básico de integración en organización terrorista

y aprovecho para recordarle ya que a usted le ha gustado la apelación a organismos internacionales que dicha

y la sentencia también por ser parte batasuna de la estructura de eta el señor otegi le refresco también la memoria durante la fase de juicio oral tal y como dice la propia sentencia no condenó ni tan siquiera reprochó

el nuevo tiempo no significa impunidad no significa pagar por los delitos cometidos

que fundamenta la estancia en prisión de esas personas y el cumplimiento de sus condenas

no son suficientes lo que ocurre señor urkullu es que ustedes quieren una justicia a la carta y ya que reclamaron el adjetivo se lo voy a decir una justicia abertzale distinta de la del resto de los mortales

entonces la justicia parece que no funciona y señor lehendakari pone de manifiesto un planteamiento que es una visión peculiar de la democracia

usted ha dicho no es nueva y que ya hay declaraciones al respecto estrategia que responde a esa querencia natural de inclinarse por esas tesis que tanto gustan a algunos de presentar a la democracia española como una democracia de baja calidad

y justificar aunque sea a medio plazo su proyecto de ruptura o responde a una estrategia igual o más preocupante

del mundo de la izquierda radical sí señor urkullu aunque no le guste contentar al mundo de batasuna persiguen la aclamación colectiva de ese caladero electoral en que ustedes también quieren pescar voy terminando señor urkullu y aprovecho para reconocer que es usted

pero que su partitura cada vez es más radical y lo que le pedimos es precisamente lo contrario que no radicalice su partitura que centre sus esfuerzos y su acción en pedir

que lo hagan aquellos que todavía hoy sentados aquí no reprochan la acción de quienes hicieron sufrir tanto a los vascos porque de no ser así señor urkullu puede que a otegi y los suyos le den

pero en cualquier caso yo hablo de criterios y de principios que nos permitan avanzar en la línea propuesta por el plan de paz y convivencia del malestar al bienestar

y que desde la primacía de la realidad defiendo también en dos mil trece he respetado las sentencias siempre y las voy a respetar ahora bien tendremos que admitir que la realidad ha cambiado que lo ha hecho a mejor que tenemos un deber social de normalización y de conciliación que ello no obsta

tantas veces he hecho siga insistiendo en la necesidad del desarme del abandono definitivo de las armas del reconocimiento del daño causado de la memoria a las víctimas de terrorismo pero insisto también que estamos ante una oportunidad

tendremos que aceptarlo asumirlo y obrar en consecuencia para que las cosas que han cambiado a mejor

gracias presidenta señor lehendakari otra pregunta en relación al

nos han presentado dentro del eje dos se incluye la iniciativa ocho denominada hitzeman en la que se propone diseñar e impulsar en materia de reinserción un programa vasco propio de reintegración social

facilite o en su caso agilice el informe favorable a los procesos de reintegración social también propone que la política penitenciaria constituya un factor de consolidación de la paz y la normalización social

dependerá de la capacidad que tenga la iniciativa de tejer consensos entre instituciones y entre los propios afectados tejer consensos entre instituciones y entre los propios afectados suponemos que refiriéndose a los presos condenados por graves atentados terroristas consensos

y además acaba con un amplio catálogo de las clásicas reivindicaciones históricas ya de su gobierno y del mundo nacionalista

transferencia de la competencia de prisiones la excarcelación de presos enfermos

la normalización se dice del acceso a beneficios penitenciarios continuidad de talleres de convivencia y encuentros restaurativos y medidas de sentido común dicen para los reclusos con condenas relacionadas con actividades políticas antes ilegalizadas según ustedes todo esto nos traerá

se merecen que se facilite o agilice o su integración social aún cuando rechacen colaborar con la justicia

aún sin resolver creo que la pregunta es clara concisa y concreta gracias lehendakari

legebiltzarburu andrea señor maneiro las personas presas

que la legalidad y el consenso interinstitucional y político hacen posible el programa hitzeman del plan de paz y convivencia establece el marco de actuación en el que el gobierno vasco quiere situar su política penitenciaria este marco viene definido

legalidad y consenso la legalidad y el consenso facilitan la integración social de las personas presas pero me referiré a la legalidad y al consenso comienzo por el principio de la legalidad señor maneiro el programa hitzeman atiende lo que dicta

sobre competencia en materia de política penitenciaria el artículo veinticinco de la constitución sobre reinserción y finalidad resocializadora

sobre el acercamiento de presos el cuatro punto dos del reglamento penitenciario sobre beneficios penitenciarios

punto dos para agilizar procesos de reintegración social ese es el principio de legalidad

el plan de paz y convivencia y el principio de consenso adaptar la política penitenciaria a la nueva realidad es una actuación responsable legal y adecuada el gobierno vasco considera que esta adaptación se debe realizar buscando el máximo consenso posible entre instituciones señor maneiro

de un modo unilateral a buscar el consenso con las instituciones vascas en todas aquellas materias sensibles
para la paz y la convivencia esto es lo que queremos decir en el plan de paz y convivencia eskerrik asko lehendakari jauna

sí gracias presidenta señor lehendakari

en el turno de réplica pero la pregunta era clara y concreta en relación a si estos presos

cuando todos ellos sin excepción se niegan a colaborar con la justicia para resolver

esta es la pregunta que yo le hago y en concreto tanto que ustedes hablan de presos presos presos y más presos y política penitenciaria y yo le quiero hablar de víctimas de las víctimas y del derecho

qué proponen ustedes para resolver los trescientos veintiséis crímenes cometidos por eta

en concreto si es que ustedes proponen algo nosotros décimos que se les exija a los presos de eta la colaboración con la justicia para que se puedan resolver estos trescientos veintiséis

y que se condicione no solo el acceso a cualquier tipo de beneficio penitenciario sino incluso el acceso a cualquier plan de reinserción a su colaboración

ustedes de acuerdo o no porque ustedes hablan continuamente de presos de presos y de presos y de política penitenciaria pero lo importante supongo yo que son las víctimas

y sin embargo quieren acceder a beneficios penitenciarios por lo tanto exigencia

antes de acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario o plan de reinserción esto es lo que usted y su gobierno deberían poner encima de la mesa gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sinceramente espero que la finalización de este período de sesiones nos sirva para que de cara al inicio del próximo período de sesiones vengamos todos con otra disposición entendiendo que estamos ante un nuevo tiempo y sin hacer tergiversaciones y sin hacer interpretaciones interesadas y

calificarlas de maliciosas en lo que pueda ser los planteamientos que este gobierno hace en relación a determinados derechos a determinado cumplimiento de una legislación existente y contraponiéndola a lo que pudiera ser la memoria por ejemplo en este caso de las víctimas del terrorismo mire sobre el compromiso del gobierno con las víctimas del terrorismo le voy a decir claramente el gobierno

o por las víctimas del terrorismo desde la propia secretaría general de paz y convivencia también el gobierno hace suyos además de los principios y directrices que el dieciséis de diciembre

de las naciones unidas sobre el derecho de las víctimas en el marco de los derechos de verdad justicia y reparación

y lo que supone la aplicación del reglamento penitenciario en su artículo cuatro punto dos sobre beneficios penitenciarios y la vinculación que tiene con la colaboración con la justicia

a preguntarme sobre esta cuestión que ya está respondida en la primera respuesta que le he ofrecido

señor maneiro insisto también el informe base de vulneración de derechos humanos que hemos presentado es plenamente coincidente con el espíritu y con la letra de los principios de naciones unidas sobre los derechos de las víctimas a las que usted alude

establecer mecanismos de investigación que clarifiquen los atentados de eta no esclarecidos el gobierno vasco ha hecho suya esta declaración eskerrik asko

mila esker presidente andrea legebiltzarkideok señora uriarte el programa de gestión solidaria de libros de texto surgió de una iniciativa parlamentaria del año dos mil cinco

desde dicha fecha el programa ha ido extendiéndose a los distintos ciclos de primaria y primero y segundo

desde sus inicios dos han sido los objetivos claros del programa uno el educativo

en valores tales como el cuidado de los bienes culturales la corresponsabilidad el sentido de la solidaridad y el desarrollo sostenible dos ayudar a las familias a reducir el gasto derivado de la adquisición del material escolar en fechas recientes su departamento señora

para la gestión de este programa durante el curso dos mil trece dos mil catorce instrucciones que he de decirle llegan muy tarde tardísimo y que han generado un profundo mal estar en los centros y en las familias estas instrucciones prevén la no reposición de los libros de texto del segundo y tercer ciclo de educación primaria lo que supondría

la utilización del material correspondiente al segundo de dichos ciclos por seis cursos consecutivos seis cursos consecutivos el quinto curso como usted sabe fue responsabilidad mía es decir los libros de texto

para cuatro años en el quinto curso en conversaciones con las familias en marzo les pedimos un quinto curso

puesto que la situación económica era comprometida y ciertamente por primera vez y en un contexto en el que las ayudas a la escuela pública eran numerosas las familias lo comprendieron lo aceptaron

esta vez se les pide por segunda vez un sexto curso sexto consecutivo y además y además no se prevé que las familias puedan dejar de hacer la aportación económica calculada para el periodo de reposición la no reposición tiene varias

la no reposición durante este curso del material para el segundo ciclo de educación primaria supone que los libros utilizados por niños y niñas de ocho y nueve años

durante cinco cursos como ya le he dicho vuelvan a ser reutilizados y según la opinión generalizada de los centros

el nivel de deterioro de dicho material escolar es alto y su no renovación

en primera instancia a los propios centros el problema porque aquellos centros que están verdaderamente comprometidos con los objetivos del programa que los hay

incluso con recursos propios del centro un alto número de ejemplares si quieren evitar que muchas familias en muchos problemas tengan que hacer un esfuerzo importante para estos libros de texto para sus hijos e hijas esta presión sobre los centros ocurre además en un momento en el que señora uriarte debido al recorte que usted ha producido en el capítulo segundo y la manera

teniendo en cuenta los remanentes lo cual sin duda ha supuesto una vulneración clara del principio de autonomía de gestión económico financiera de los centros al mismo tiempo que por esa vía de los hechos ha venido usted a castigar la propia capacidad de organización la propia capacidad de ahorro digo que cuando llega esta nueva medida es en este contexto de escasez en la que ha de aplicarse pero con posterioridad a las citadas instrucciones el director de centros envió a los centros para justificar además la decisión del departamento indicando que en el presupuesto de dos mil trece presupuesto prorrogado de dos mil doce está reflejada la partida correspondiente al primer ciclo de enseñanza primaria por lo que es técnicamente imposible

lo que olvida esta nota por ser benevolentes se lo digo

es que en el proyecto de presupuestos presentado al parlamento a este parlamento por su gobierno

era menor que la del presupuesto dos mil doce

es decir su propio presupuesto señora ya anunciaba

que el presupuesto de dos mil doce por lo tanto es renunciable el tener que buscar la mascarada de que

personalmente no me preocupa allá ustedes allá su equipo allá usted misma

exclusivamente suyas exclusivamente suyas y que realmente es mucho más

cuando las cosas se dicen con total claridad este gobierno es capaz de buscar alternativas para otros muchos programas que no estaban

también además la mencionada nota continúa indicando curiosamente que la prioridad del departamento durante el año dos mil trece ha sido la del mantenimiento de la plantilla

lo que ha supuesto la disminución de recursos económicos para otros capítulos la educación señora

requiere el mantenimiento de las plantillas como nosotros mismos lo hacemos lo hicimos enfrentando nada menos que el real decreto de rajoy que hacía referencia a esto

pero usted ha dado un recorte muy muy importante a las políticas que afectan a la educación pública a la escuela pública y yo le digo que esto no puede recaer

ni en los centros ni en las familias y que usted debe arreglarlo téngase en cuenta

que no se contempla la reposición de los libros de texto de segundo ciclo de primaria al mismo tiempo usted

al de los libros de texto que las becas y las ayudas han disminuido que la promoción educativa tiene una disminución del treinta y uno por ciento y que

usted tiene que hacer un esfuerzo para arreglar este problema pero la pregunta la interpelación que le hago es qué prioridad otorga

y qué proyecto tiene para el conjunto de la legislatura habida cuenta
que estamos en un contexto de crisis nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá anderea eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andereak dauka hitza

compartiendo con usted las bondades del programa de gestión solidaria de libros de texto en material curricular para el alumnado

supongo señora celaá que tampoco tuvo que ser fácil para usted

porque conviene aclarar como usted ha dicho que fue el anterior ejecutivo quien modificó la resolución por la cual se fijan las instrucciones del programa añadiendo en el texto como mínimo al referirse al periodo de utilización de cuatro cursos escolares bere garaian

arazoa zein den la renovación del material correspondiente al segundo ciclo de primaria supone un coste adicional de dos millónes y medio de euros

nos veríamos inmersos en un incremento total de cinco millónes de euros huelga decir que además de las buenas intenciones que no dude que las tenemos resulta imprescindible asumir la realidad económica que atravesamos

entendemos que los posibles inconvenientes de esta medida no condicionan la calidad del servicio educativo que se ofrece es más consideramos fundamental avanzar de manera decidida hacia el tránsito de los libros de texto tradicionales

será de manera progresiva nos llevará su tiempo y en ningún caso

no obstante la introducción del programa eskola dos punto cero

puede requerir una formulación global de ambos se ha realizado una importante inversión para la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el espacio educativo mediante el programa eskola dos punto cero la dotación de la infraestructura tecnológica y de conexión wifi a internet

para continuar por la senda de la modernización iniciada en este sentido estamos realizando avances de manera coordinada con otras comunidades autónomas con el objeto de alcanzar una solución en torno al denominado libro digital asimismo

las tecnologías de la información y la comunicación a las tac tecnologías del aprendizaje y el conocimiento se trata de cambiar el aprendizaje de la tecnología

de que disponemos al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento así mismo

materiales de creación propia capaces de adaptar los materiales existentes a la realidad de cada centro ekintza guzti hauek martxan daude

en fin con su retórica lo que ha venido a hacer es reiterar la descripción de las cosas que hacíamos en la pasada legislatura

con el programa de materiales de libros de texto por lo tanto haciendo pasar progresivamente lo físico a lo digital componiendo un puzzle que lo abarcara todo pero es que lo que verdaderamente desazona señora uriarte es que usted se ha dejado

impresionante en la educación pero impresionante sobre todo en lo que afecta a la educación pública a la escuela pública porque claro me habla de materiales de creación propia

mire usted en sus previsiones no sé si se pensara gastar lo mismo que ha heredado de la prórroga presupuestaria pero mire usted en sus previsiones en las que trajo a este parlamento lo que usted tenía no llegaban eran ciento y pico mil euros no tiene nada que ver me está hablando usted

para la reforma del decreto del bachillerato con la religión de ahí lo puede sacar

usted me habla de una formulación global con eskola dos punto cero nosotros en la pasada legislatura vinimos a consumir cuarenta y ocho millónes de euros en el programa eskola dos punto cero

por tanto qué es lo que va a hacer está bien su discurso su discurso es el mismo que nuestro discurso pero dónde está el recurso fíjese

se han deteriorado en becas en concreto usted va a consumir en el año dos mil trece un siete por ciento de lo que es el cómputo total de la beca y esto que significa la beca no solamente es importante la cuantía que se oferta a la familia es importante el cuándo se oferta esa ayuda

y eso por no hablar de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los centros señora

inesperado es decir que se le miren los remanentes a un centro

con delicadeza porque quiere abordar otro proyecto o porque tiene que hacer un pago en otra fecha y que de pronto se vea que sus atribuciones para este año

esto es un entrar en la capacidad de organización propia de los centros

por no hablarles de otros programas al inglés que estaba

ustedes le han recortado un cuarenta y cinco por ciento nada menos entre

y de lujo nada es igualdad es plena igualdad y entonces yo le digo que efectivamente nosotros hicimos

que el gobierno sea claro es muy importante nosotros le pedimos el quinto curso consecutivo como un esfuerzo a las familias y se lo hicimos y se lo anunciamos en marzo y lo entendieron y lo compartieron qué ocurre que las familias ahora no entienden no comparten lo que usted les está diciendo a finales de mayo y en junio no lo entienden no lo comparten no saben a donde va

porque a diferencia de lo que decía la instrucción de su dirección de centros dicho sea de paso

de dos mil doce desde luego no hace referencia a los libros

a la gestión de los libros de texto es una partida para gestión de libros de texto por lo tanto bien podría ser atribuida a primaria

gestión y transferencias en ejecución son posibles conocemos como se administra el presupuesto pero yo le digo las familias le están pidiendo esto a usted que lo arregle las familias están pidiendo a los centros que no cobren y están pidiendo a las familias que no paguen este es un desencuentro un desencuentro que usted tiene que arreglar y tiene que arreglarlo con imaginación tiene que arreglarlo además económicamente

está siendo preterida en estos seis meses de legislatura en muchas partidas

el gobierno pasado también tuvo que gestionar en una situación de crisis profundísima

que ustedes hicieran sus prioridades en la legislatura pasada y en el año pasado pero lo cierto es que lo que hemos heredado la prórroga presupuestaria no implica que hayamos heredado la misma cantidad de dinero estamos hablando de que disponemos mil quinientos millónes de euros menos

y partimos de ahí a la hora de tomar decisiones y hacer priorizaciones entonces no podemos comparar una situación con otra

acatación de la sentencia sobre la asignatura de religión

no supone que tenga que haber un coste hay formas también de hacerlo y de hecho así se va abordar eta momentuz

es decir en estos momentos en los cursos quinto y sexto de primaria vamos

que participan en este programa vamos a tener en cuanta los años de vida de los libros a la hora de calcular la aportación

en lugar de tener que pagar el veinte por ciento como hasta ahora esa cuota se reduzca en un margen entre un cinco y un diez por ciento del valor en función de la antigüedad

como cuota de mantenimiento y en lo que usted decía

prevista en el proyecto de presupuestos de dos mil trece si hacemos la comparativa de lo que estaba en el año dos mil doce y en este proyecto del dos mil trece en el presupuesto del dos mil doce fueron dos millónes ochocientos once mil doscientos y en el proyecto de presupuestos dos mil trece figuraba

por lo tanto no es cierto lo que usted ha dicho edozein kasutan

presidente andrea a la pregunta relativa a nuestra intención de adoptar medidas inmediatas para la protección integral de praileaitz le diré en primer lugar que el gobierno vasco se ha mostrado

con este objeto precisamente se aprobó el decreto ciento veinte barra dos mil siete por el que se califica como bien cultural

por tanto sí tenemos intención de continuar velando por la adecuada conservación de la cueva

para después poder actuar en conciencia mientras tanto continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la diputación foral de gipuzkoa para realizar el adecuado seguimiento y control de la cueva y sus pinturas y velar por su adecuada conservación en cualquier caso

ha caducado y que en la actualidad el marco vigente es el establecido mediante el decreto ciento veinte barra dos mil siete

y no tenga ninguna duda de que volveremos a actuar con la independencia de su coste económico

su departamento envió a los centros una comunicación indicando que para el nuevo curso para el curso entrante entre las novedades el alumnado de bachillerato podría elegir entre la asignatura de religión y una asignatura alternativa concretamente decía que

alternativa lo que produjo desde luego una gran desazón en los centros educativos mucho mal estar muchas preguntas y muchísima especulación

hablando qué currículum qué profesores qué era esto

en la que se habló ya de atención educativa por tanto cuando menos cabe indicar que los centros se han sentido

en esta cuestión sino profundamente desinformados por parte del departamento que usted dirige máxime cuando esa desinformación es aún más grave por lo que se está transmitiendo vía instrucciones no está soportado

oficial que no prevé dicha materia alternativa con lo cual el departamento está actuando con una escasísima seguridad jurídica por tanto no puedo sino reprochar en primera instancia la forma en que su departamento ha trasmitido una información relevante a los centros y le pregunto

usted ha transmitido esas comunicaciones

efectivamente por parte de este departamento se procedió al envío de una comunicación a los centros educativos indicando como novedad reseñable que el alumnado de bachillerato podría elegir entre la asignatura de religión y una asignatura alternativa ello efectivamente como usted bien afirma en la parte justificativa de su pregunta es un incumplimiento obligatorio de la sentencia del tribunal supremo

por lo tanto el tratamiento de la enseñanza de religión en el bachillerato variará como consecuencia de la aplicación de la sentencia del veinte de julio de dos mil doce del tribunal supremo que declaró disconforme a derecho y nulos la disposición adicional primera

por el que se establece y se implanta el currículo de bachillerato en la comunidad autónoma del país vasco en lo que se refiere a la enseñanza de religión beraz

esto es el alumnado que no estudie religión deberá cursar

sí señora uriarte la verdad es que he de decirle con tristeza

de la voluntad eclesiástica en la educación vasca que está usted tolerando empieza a ser preocupante y desde luego enteramente inaceptable ya no solo se trata de la interpretación abusiva que usted hace del misio canónica como pasaporte para que los profesores de religión entren en las listas

en desigualdad con el resto de los profesionales se trata además de que usted está convirtiendo por la vía de los hechos lo que es derecho de alguno en obligación para todos usted ha puesto en marcha efectivamente la modificación del decreto de bachillerato en pretendido cumplimiento de la sentencia del tribunal supremo yendo más allá

impone una alternativa espejo a la religión en bachillerato ni siquiera señora sabe que lo soluciona a través de una optativa usted sí usted pone la atención educativa

su medida es desde luego ilógica y es inaplicable me va a decir usted cómo va a sostener a un noventa y siete por ciento del alumnado de dieciséis diecisiete años a una atención educativa inespecífica mientras el resto el tres por ciento de alumnado está cursando la religión dígame cómo lo va a hacer pero es más usted pierde

y su medida va a costar por lo menos dos millónes de euros eso en sus propios términos mire usted hay soluciones mucho más imaginativas el real decreto

le da a usted la pauta para poder arreglar esto yo le sugiero una respuesta mucho más imaginativa haga el favor de reproducir ese real decreto

no sostenga el plan que usted pretende mantener para el bachillerato porque sencillamente es inaplicable
en nuestros centro educativos nada más y muchas gracias eskerrik asko

señora celaá ante la mencionada sentencia de veinte de julio

la consejera de educación universidades investigación del anterior gobierno vasco

por orden de catorce de agosto dispuso su cumplimiento

así se elaboró un primer proyecto de modificación del decreto veintitrés barra dos mil nueve de tres de febrero con la finalidad de iniciar su tramitación

por usted misma dicho primer proyecto de modificación de decreto

la materia alternativa era un aspecto fundamental que no había sido tenido en cuenta del proyecto por ello y basándonos en informes jurídicos elaborados por el personal del gobierno vasco nos vemos obligados ahora en la tramitación de un segundo proyecto de modificación que cumpla en todos sus extremos con la citada sentencia de esta manera y dadas las fechas en la que nos encontrábamos de planificación

hubo que incluir en los modelos de prescripción de bachillerato la posibilidad de que el alumnado eligiera entre religión o una asignatura alternativa ya que la sentencia obligaba al establecimiento de una asignatura alternativa a las enseñanzas de religión en cumplimiento de los acuerdo y en ese estado del mil novecientos setenta y nueve

en resumen el departamento que dirijo no tiene otro propósito que el de ejecutar la sentencia del tribunal supremo eskerrik asko eskerrik asko

erkoreka jaunari habla usted de negociación

a los sindicatos que vayan a la vía judicial curiosa visión de la negociación que tiene usted en la mesa general

impuso un decreto no es que se hayan sentado ustedes con los representantes y las representantes de los trabajadores del sector público

impusieron un decreto un decreto que por cierto la mayoría de esta cámara pidió que se retirara eso no es negociar eso no es que haya dos partes

y las dos tengan que ceder para llegar a un acuerdo eso es

y es muy lógico cuál es la postura de los sindicatos porque se sienten que son ellos los trabajadores los que están pagando las consecuencias de esta crisis una crisis que no han creado los trabajadores y está calando ese mensaje

trabajadora de este país solo hay que ver cuáles han sido los resultados de las últimas elecciones sindicales que ha habido en el ámbito de la administración vasca

cuál ha sido el sindicato mayoritario y cuál ha sido el que ha subido

el número de representantes aquellos sindicatos que en este momento de recortes dicen que ni un paso atrás ni para coger impulso porque quien no ha provocado la crisis
no tiene por qué pagarla eskerrik asko maeztu jauna eta erantzuteko

me resultaría sumamente fácil citar como tantas veces le he hecho como hasta ahora todos los supuestos en los que eh bildu dice una cosa

y yo creo que no estamos aquí para aburrir a nadie eso ya está sus contradicciones son una evidencia que también

a conocer por sus votantes y también por los sindicatos que saben que ustedes dicen una cosa aquí y donde gobiernan

kontua da mire mi responsabilidad es efectivamente gestionar los recursos públicos del gobierno vasco y desde ese punto de vista durante el mes de mayo hemos convocado a los sindicatos a la mesa general en dos ocasiones con temas de mucha importancia

que el complemento retributivo de la incapacidad temporal para contingencias comunes la regulación de supuestos de excepcionalidad previstos en la última reforma del estatuto básico del empleado público permiso de atención de hijos menores afectados por

permiso retribuido para acompañamiento de menores externalización limitada de servicios públicos todos estos temas los hemos puesto sobre la mesa los sindicatos han preferido suspender la conversación en la mesa general no las han roto pero las han suspendido yo confío en que en el mes de septiembre vuelvan a reunirse y que antepongan

a sus intereses tácticos estratégicos del momento los intereses los

puntuaren seigarren atalean esaten du el contratista estará obligado a que el trabajo tanto en su empresa como en las empresas que subcontrate se desempeñen en condiciones dignas

del departamento al que se refería como usted sabe

españa y evidentemente la comunidad autónoma estamos dentro de europa estamos dentro del euro

y hay que adoptar una serie de medidas que se adoptan en europa y que se trasladan a todos los estados pertenecientes en este caso

es evidente que la crisis económica del año dos mil ocho agravó los desequilibrios financieros de todas las administraciones públicas la unión europea tomó determinadas decisiones para que eso afectara lo menos posible

y a todas las economías y el caso es que tenemos la normativa que tenemos plasmada en españa en la ley de estabilidad presupuestaria para consolidar el proceso de consolidación fiscal y reducción de deuda pública esa propia ley en su artículo tres dice que los presupuestos que todas las administraciones incluido el gobierno vasco elaborarán y se ejecutarán conforme al marco de estabilidad presupuestaria y hay un artículo diez que obliga a todas las administraciones públicas a adecuar la normativa presupuestaria a los principios de la ley

presupuestaria es decir a los principios de estabilidad y a los principios de sostenibilidad

esta comunidad autónoma evidentemente no tiene trasladado a su normativa presupuestaria

pero si nos trasladamos a la propia ejecución ya del presupuesto de este año vigente tenemos la paradoja siguiente y el señor consejero

probablemente o no creo pero por ejemplo en la ejecución presupuestaria treinta y uno de mayo figura presupuesto inicial presupuesto actualizado que es el que teóricamente estamos ejecutando y por ponerle un ejemplo de una partida que es el de la deuda figura presupuesto actualizado treinta y uno de mayo

porque además así lo trajo en el proyecto de presupuestos que luego retiró que asciende pues a más de cuatrocientos cuarenta millónes de euros por lo tanto hay un desfase de más de doscientos sesenta millónes de euros sin embargo nosotros estamos manejando un presupuesto

no ya a los criterios de déficit sino tampoco está respondiendo a la realidad de nuestra economía es decir todos los que estamos aquí sabemos que este año el gobierno vasco dispone

al presupuesto que ustedes a treinta y uno de mayo consideran actualizado

por lo tanto lleva este gobierno prácticamente seis meses

salvo aquella inicial de traer el presupuesto que se trajo y que luego se retiró por lo menos nosotros no tenemos conocimiento a través

para adaptarnos no ya a los principios europeos sino a la realidad económica y financiera que tenemos este año en la ejecución del presupuesto por eso es por lo que nosotros

alguna intención de adecuar la prórroga del presupuesto que tenemos en estos momentos a la realidad y a esos principios o no la tiene o piensa este gobierno seguir hasta final de año hasta el treinta y uno de diciembre con un presupuesto inflado en más de mil doscientos millónes de euros esa es la pregunta que le tenemos que hacer y por supuesto

a la normativa genérica y general que tenemos de toda la normativa presupuestaria muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

gracias señora presidenta señor damborenea me plantea usted dos ámbitos de debate

a la normativa de estabilidad presupuestaria de nuestro sistema legislativo

tenemos un marco que deriva sobre todo de la nueva gobernanza de la unión europea

el paquete del six pack el conjunto de normas que abordan el endurecimiento y la modificación del pacto de estabilidad de crecimiento en segundo lugar otro paquete de normas que abordan el cambio de orientación en la política sancionadora

al cambio en cuanto a los criterios de vigilancia hay otro quinto que se refiere ya a los marcos presupuestarios

en marcha que en el ámbito de la gobernanza económica se conocen como los que hacen referencia al desarrollo de la gestión presupuestaria juntamente con ello que tenemos tenemos el pacto fiscal también conocido por otros como el pacto presupuestario

de un acuerdo intergubernamental que no tiene características de modificación del tratado de funcionamiento de la unión europea y que establece unos márgenes

los acuerdos del pacto fiscal o el pacto presupuestario

fueron en paralelo pero establece la posibilidad de un déficit estructural en situaciones

estabilidad presupuestaria nuestra exigiendo

déficit estructural cabe en determinados supuestos de reformas económicas o en supuestos de grave recesión o catástrofes la posibilidad de un déficit estructural máximo del cero coma cinco

sabe usted que la economía tiene unos ciclos los ciclos normales de la economía

de lo que se trata en definitiva es en lo que afecta al papel del sector público que el sector público pueda

económico de manera que se acerque el crecimiento de la economía al crecimiento potencial del producto interior bruto de la economía española y la economía vasca pero como la economía no solamente funciona con el crecimiento potencial evidentemente los ciclos hacen que haya diferencial deficitario en la parte

alcista del ciclo y es cierto como usted decía que eso supone el funcionar con unas reglas de

y sostenibilidad financiera que a su vez van complementadas por un conjunto de principios

concretizan y desarrollan estas dos grandes reglas y en tercer ámbito hay otra regla que es la regla del gasto que es la que hace referencia a que

quitando lo que es el gasto de desempleo el gasto correspondiente a transferencias ordinarias de financiación de comunidades autónomas en nuestro caso esos serían unos temas si se podría asimilar al desempleo

no pueda superar la tasa de crecimiento establecida para la economía española se mide con la economía española y no con el crecimiento la tasa de crecimiento que podíamos medir nosotros también

esas son efectivamente las reglas de funcionamiento y luego desarrolladas

de presupuestos para el año dos mil trece que al final no se aprobó en la cámara en la adecuación al principio de transparencia sobre todo en la materia de los ajustes presupuestarios de contabilidad nacional que son los que mejor

usted lo sabe está por primera vez en la historia de la cámara la información presupuestaria viene ajustada a esos parámetros con qué finalidad con la finalidad de que en base al principio de transparencia ustedes la cámara los representantes legítimos puedan conocer con mayor exactitud el crecimiento del objetivo de nuestra estabilidad presupuestaria eso lo hemos hecho pero es cierto que

poner en marcha o disciplinar esas reglas que ya he dicho de la gobernanza económica que derivan de los paquetes el presupuestario y

modificación del pacto de estabilidad con el acuerdo intergubernamental del pacto de fiscalidad y que todo eso nosotros el martes vamos a aprobar el calendario legislativo en ese calendario legislativo nuestro departamento el departamento que yo dirijo tiene un proyecto legislativo de modificación del régimen presupuestario vasco

ahí tenemos intención de insertar las reglas

ese compromiso lo anuncio en el calendario legislativo del gobierno habrá

que tenemos que funcionar con los parámetros del contexto que hace unos instantes he indicado

usted también al funcionamiento actual

en la situación de prórroga sabe usted que tenemos dos características por un lado

actualizados del presupuesto del dos mil doce pero en el ámbito de los ingresos tenemos la previsión de ingresos por el consejo vasco de finanzas hemos actuado también y estamos actuando aunque no tenemos en vigor el acuerdo suscrito sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria del dos mil trece con un criterio de prudencia y es presentar los presupuestos

de la economía vasca eso a qué nos supone nos supone como usted bien sabe que tengamos un presupuesto

y que no fue aprobado por la cámara no tuvimos el apoyo suficiente y al final lo retiramos pero tenemos el compromiso señor damborenea que ya lo hemos hecho público nosotros lo ha hecho público también el lehendakari de cumplir con el objetivo de

las puertas de conocer la fase final de semestre europeo que está regulado en el pacto de estabilidad y crecimiento intervienen el consejo

vamos a ver qué ocurre ahí en función de lo que allá ocurra nosotros tendremos un objetivo de estabilidad presupuestaria para este año dos mil trece

en fin pongamos la hipótesis de que no haya relajación ninguna no parece que sea lo obvio porque ya hay una recomendación en este momento en la comisión pero que tiene que pasar los otros dos pasos previstos de tramitación en el semestre europeo

nos ajustaremos el año dos mil trece a terminar el cierre del ejercicio presupuestario

el objetivo señor damborenea es cumplir es cumplir con ese objetivo

que si ese objetivo fuera con el que presentamos los presupuestos evidentemente

ajustarnos en el desarrollo y en la ejecución presupuestaria del dos mil trece al proyecto de presupuesto si las reglas de la estabilidad presupuestaria

nos ajustaremos en el presupuesto dos mil trece a las reglas de la estabilidad que acordemos que entendemos que serán una décimas superiores a las que inicialmente tenemos con qué finalidad y eso es lo que lo quiero terminar con mi primera intervención con la finalidad de que

también es importante tener unas cuentas públicas saneadas es una cuestión que nosotros lo hemos cumplido hasta la gran recesión en la que entramos ahora estamos en la segunda fase

de la segunda subfase de la gran recesión que entramos el segundo

pues bien sabía sabe usted que todos esos años anteriores cumplíamos perfectamente

también lo vamos a cumplir y tenemos el objetivo de bien sea el objetivo déficit de un calibre o de otro adaptarnos a ello y por lo tanto

los centros de gasto del gobierno saben que tienen que ajustar sus políticas de gestión económico financiera a esos parámetros inicialmente el cero coma siete por ciento del producto interior bruto y

una ampliación del objetivo déficit

se amplíe y que acordemos bilateralmente entre el gobierno central y las instituciones del país vasco con esa filosofía estamos haciendo la gestión económico financiera del presupuesto con la finalidad de cumplir la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera

señor consejero bien en la primera parte

lo cual me parece bien como no podía ser de otra forma y en la segunda parte pues es donde yo me quedo yo no tengo ninguna duda de que usted y este gobierno

no tengo ninguna duda pero yo lo que le estoy diciendo a usted si cuando usted me decía y tenía razón

se hace un ejercicio de transparencia pero se retira hoy esa transparencia no existe por qué porque hoy lo que tenemos porque este gobierno

la prórroga de presupuestos tenemos el presupuesto literal del año pasado y usted sabe como me acaba de volver a decir y que todos sabemos que es un presupuesto al que le falta la realidad del dinero que lo tiene que sustentar que pueden ser mil cien mil doscientos o mil trescientos depende al final la recaudación si es más es menos o lo que sea

cuatrocientos pero en cualquier caso van a faltar cerca de ochocientos millónes

si este gobierno no toma ninguna decisión de adaptar el presupuesto que está ejecutando la ley que está este gobierno ejecutando hoy dice que ustedes cuentan con más de mil doscientos millónes de euros de los que verdad cuentan y sin embargo

hay partidas que según ustedes y le he puesto solo la del ejemplo de la deuda es decir todos sabemos que usted tiene que pagar este año más de cuatrocientos millónes de euros sin embargo tiene un presupuesto que solo le autoriza pagar ciento ochenta

porque es la primera obligación del gobierno usted tendrá que hacer alguna modificación del presupuesto tendrá que adaptar las partidas a ese presupuesto ese ejercicio de transparencia pero no solo en la partida de la deuda en todas las partidas

al presupuesto que está ejecutando el gobierno vasco es decir entre la legalidad vigente en materia presupuestaria está la ley que está ejecutando en estos momentos

este gobierno y ustedes en algún momento tendrán que tomar una decisión de adaptar

a la legalidad y a la realidad que es la segunda parte de mi interpelación usted me dice que la normativa general ya la van a modificar para decoro de los principios europeos que efectivamente hay que hacerlo pero también hay que hacerlo

la ejecución o usted va a pagar la deuda sin consignación presupuestaria

y las demás partidas porque tienen también más partidas que si se han incrementado

al ver la ejecución se ve que algunas se han incrementado entonces este gobierno una cosa es el ejercicio de transparencia que hay que realizar

pero es que nosotros hoy tenemos la más oscurantista de toda europa porque tenemos una que no responde absolutamente nada

ni a la realidad del dinero con el que cuenta este gobierno y por eso nosotros también estábamos preguntando no solo por la normativa presupuestaria general por el texto refundido también por esta ley piensan ustedes

la ley prorrogada que están teóricamente ustedes ejecutando a esos principios de transparencia a esos principios de estabilidad y a la realidad económica

señora presidenta señor damborenea evidentemente

porque usted verá los datos de ejecución presupuestaria en fin nosotros cumplimos con las normas que tenemos de consolidación

usted ha visto los datos recientes del ministerio de economía de las comunidades autónomas en fin

pero en esta fase del año no son todavía importantes por qué

el cierre del ejercicio que se produce fundamentalmente en los dos últimos meses del año son donde se produce la contracción de las obligaciones y la contabilización de las mismas

gran trascendencia a esos datos que uno podía salir airosamente

la contracción de las obligaciones y su contabilización se realiza en la fase final del año o en los tres primeros meses del año siguiente y por lo tanto

sí le quiero decir una cosa y es que nosotros estamos actuando con toda la transparencia estamos mandando toda la información correspondiente al parlamento y

que vamos a adaptarnos al cumplimiento del objetivo de déficit es decir que las obligaciones reconocidas de año vamos a intentar que sean de tal número

el déficit que se acuerde para el año dos mil trece eso es lo que vamos a hacer

la intención del gobierno es cumplir con el objetivo que finalmente se acuerde en el marco de gestión político institucional que antes he dicho y eso lo va a ver usted y lo puede seguir viendo en las mismas condiciones que veía usted eso

el año dos mil once y el año dos mil doce que por cierto usted era corresponsable co gobernaba en la asunción de ese endeudamiento que se produjo durante tantos años y usted además lo desde la tribuna pues el endeudamiento que se produjo era el responsable económico de su partido en la materia

y es el mismo grado de información que se pasa el mismo grado de información lo puede ver usted y comparar el que podía darse en junio de dos mil doce o en junio del dos mil trece y bueno pues al final el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria

con la medición de los derechos reconocidos

reitero la intención del gobierno es cumplir con ese objetivo

esa es la finalidad y ese es el objetivo con el que

no podemos gastar más de lo que tenemos y por lo tanto el conjunto de gasto público que está

no va a ser del calibre del año anterior por qué porque es que tenemos mil ciento treinta y dos millónes menos si luego hay una modificación del objetivo de estabilidad pues la diferencia va a ser menor

pero esa es la finalidad con la que estamos actuando y esa es la finalidad

los consejeros de los diferentes departamentos del gobierno en la ejecución presupuestaria

lo va a ver a lo largo del año y la medición exacta se produce

cuando se comparan las obligaciones con los derechos y por lo tanto el cumplimiento y el rigor en la gestión económico financiera es lo que está inspirando la gestión del gobierno

no tenemos esos ingresos que tenía el presupuesto del año dos mil doce

es el que presentamos el pasado mes de marzo y por lo tanto si ese presupuesto es modificado en cuanto a la capacidad de endeudamiento

mayor capacidad de gasto pero siempre con la idea de intentar tener unas cuentas saneadas que respeten la estabilidad presupuestaria porque le reitero me parece y nos parece como gobierno importante tener unas cuentas públicas que cumplan

al ejercicio de la función pública y

el espíritu con el que y termino con esto en primer lugar cumplir con ese parámetro legislativo de adaptar nuestra legislación y en segundo lugar no gastar este año más de lo que tenemos adaptándonos a la de la estabilidad nada más y muchas gracias

dos meses se aprobó en este parlamento una proposición no de ley en relación a la situación financiera

en esa enmienda de transacción como usted bien sabe

un plan de competitividad y sostenibilidad que contenga medidas de choque para garantizar la viabilidad y el equilibrio operativo y por otro lado se instaba al gobierno vasco a poner en valor la infraestructura no descartando alquileres o ventas parciales de la superficie no utilizada tiene esta enmienda de transacción un tercer punto pero en fin lo que nos interesa a día de hoy son estos dos primeros

veintiuno de junio no se ha presentado ante esta cámara el plan de competitividad y sostenibilidad requerido

aunque parece que seguramente sí porque efectivamente hay una comparecencia

semana en todo caso no tenemos confirmación de que efectivamente esta comparecencia vaya a traer consigo la presentación de este plan de momento

anunció la aplicación de un ere temporal por uno o dos meses para toda la plantilla efectivamente también sabemos que los trabajadores y la dirección han llegado a un acuerdo reducción salarial del seis coma seis por ciento para los próximos años al parecer y esto es un primer asunto el director general

del recorte y en todo caso ya digo la diputación foral y el gobierno anunciaron un plan de choque para enderezar la situación económica las medidas siguen sin ser presentadas públicamente pero parece obvio que han comenzado a aplicarse

los diferentes aspectos contemplados dentro del plan en lo que se refiere a gastos estructurales y al incremento de

que todavía no ha sido presentado en esta cámara por lo tanto yo le pregunto cómo está este plan qué medidas contiene si puede explicármelas en el escaso tiempo que usted tiene

pues este próximo miércoles o si no va a ser así gracias eskerrik asko

tengo el documento el día diez de junio una solicitud de comparecencia a petición propia de esta consejera ante la comisión de desarrollo económico y competitividad para informar le leo textualmente sobre el cumplimiento de la moción consecuencia de interpelación sobre la situación financiera del bec de barakaldo en las decisiones que el gobierno vasco se plantea tomar

de la citada comisión que el próximo día veintiséis compareceré a estos efectos gracias eskerrik asko

de acuerdo señora consejera nos alegra que efectivamente esto sea así que usted vaya a presentar este plan

las características de este plan y para poder hacer las aportaciones o críticas que correspondan en todo caso quizás usted pueda adelantarnos algo en alguna pregunta anterior usted decía que tiene este plan básicamente tres objetivos por un lado disminuir gasto estructural por otro lado aumentar la actividad

son sobre todo fundamentales el primero y el segundo disminuir gasto estructural y quizás el más importante el segundo aumentar la actividad claro la pregunta es

creo que ahí está la cuestión fundamental para que el bec pueda ser viable en los próximos años y por otro lado

a la puesta en valor de la infraestructura tanto en relación a posibles alquileres como en relación a ventas parciales de la superficie

eskerrik asko presidente anderea pues como bien decía el señor maneiro

pero hoy no voy a adelantar nada más los presentaré de forma detallada el próximo día veintiséis y les comentaré exactamente de todas las labores que se han realizado para poner en valor esa infraestructura

eventos a la misma espero que esté usted presente y podamos debatir en ese momento gracias eskerrik asko

el pasado cinco de mayo se aprobó en esta cámara una proposición no de ley que

en la que se le instaba al gobierno a convocar a abrir la mesa de diálogo social

hoy es el último pleno de control quedan escasos días para acabar este periodo y no tenemos noticia

cuándo va a abrir el gobierno vasco la mesa de diálogo social eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den